sí gracias otra vez presidente mire señor aldaiturriaga

a parte de marear las comparecencias que si voy a una comisión que si voy a otra

a parte de todo podemos seguir haciendo trampas en el solitario y ustedes

jurídicas que sí todo eso sí pero esto también es ideológico y entonces ustedes

yo no comparto y creo que fueron absolutamente desafortunadas las declaraciones que hico el señor germán alonso

de las declaraciones que hizo el señor xabier agirre a quién yo no había querido nombrar

cuando se quedó en el titular del señor urkullu ni exploración ni explotación punto señor urkullu la parte que usted añadía en su blog el señor aguirre borró

y dijo queda claro tengo algo más que añadir para que quede claro y lo que pasó después de aquel debate cuando el debate terminó lo saben los que allí estaban

que si usted recrimina como yo hago las del señor alonso que opine usted

y usted dice no mejor figura la figura que mejor se considere para la protección de la zona claro cuando gobierna el pnv

que va a elegir seguro la mejor figura ahora cuando gobernaba el señor lópez no

los del pnv como siempre volvemos al rancho de siempre

mando yo cuando deciden otros vamos a dejarlo todo bien concreto

no vaya a ser que estos socialistas o otros se equivoquen mire señor aldaiturriaga pueden venderlo como quieran como decía el señor maeztu grande pequeño yo también soy de barrio sesamo pero es que ustedes están haciendo trampas

es que llega el momento de poner blanco sobre negro sí al parque natural sí o no oye

sí al fracking sí o no pero dejen de contar películas y de venir aquí en un debate de sordos en el que vienen a traernos una intervención que en muchas cosas yo puedo compartir pero que con la ley en la mano desde luego yo respeto las leyes pero es que

y entonces le digo mientras unas ideas evolucionan otras involucionan y el pnv hace siempre lo mismo tiene unas declaraciones en campaña electoral

no acabamos de venir aquí como unos marcianos es que formamos parte del juego político del país y estamos en las instituciones y estamos en los medios de comunicación y estamos en la sociedad y hablamos y escuchamos que creo que es lo que ustedes no hacen

y creen que ni les escuchan y lo que es peor no escuchan

no han escuchado a los alcaldes un momento del psoe ahora del partido popular

y a los intereses de las empresas como siempre sin hablar que el fracking volvemos a decir en euskadi es en la única comunidad autónoma que está el dinero público metido

que es lo que diferencia la preocupación y el movimiento social y político a diferencia de otras comunidades autónomas es que no tiene nada que ver intentan escabullirse del debate hablándonos de otras cosas yo no digo que el partido nacionalista vasco no se preocupe del medio ambiente de la comunidad autónoma solo faltaba

pero sin embargo no vienen al parlamento que es el foro adecuado para explicar por qué con qué criterios en qué plazos de tiempo cuánto dinero cuesta cuánto no cuesta

no ustedes solo miran quién gobierna quién decide y para quién decide y efectivamente señor urkullu esto acaba pasando factura porque donde usted puso coma y acabó explicando en su blog otros pusieron punto y ahí acabó el debate y todos los representantes políticos cada uno en su nivel de responsabilidad vale mucho lo que se dice en foros

lo que pasa que es más fácil unirte al colectivo de la mayoría que quedarte solo

me pasó a mí con el señor carro en villa suso que era más fácil decir una cosa que otra

que opinaban en contra de lo que había que defender y eso es una irresponsabilidad y una tomadura de pelo al ciudadano

usted pregunta señor maroto qué pasa con el fracking qué mueve el fracking cuánto cuesta qué intereses hay

está en toda españa y el gobierno del señor rajoy lo defiende a tope fracking sí

pero eso no se lo cree nadie y si no empezaremos el debate de la ilp y a ver qué hace el partido popular

de lo que usted aquí dice defender nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea bueno yo creo que está perfectamente claro por si alguien no lo sabía que hoy se ha venido a hablar del fracking y no de otra cosa y es que el debate de hoy no corresponde al del fracking como digo se procederá próximamente

la postura que mantiene al respecto las administraciones públicas son las que planifican el uso de los recursos naturales señorías y para ello se elaborará un plan como hemos dicho en el que se aplicará si procede

por eso con muy buen criterio la orden de la consejera de dos mil diez la señora unzalu ya advertía de esta situación y por cierto las alegaciones a que se ha referido el señor maeztu no sé usted cómo las verá pero se mire cómo se mire

del partido socialista con cierto oscurantismo por cierto y por eso pedían más transparencia

a la tramitación del expediente y también hay que decir que

también están en contra han pedido ser excluidos y aún más en el caso de vitoria gasteiz

acudieron a una reunión convocada por el propio ayuntamiento de gasteiz nosotros creemos que

en este parlamento no debemos indicar a los particulares y mucho menos a otros órganos de representación política

lo que les conviene no debemos practicar de esta cámara una especie de despotismo ilustrado suponiendo que fuesemos ilustres en la materia lo cual es mucho suponer el lema de todo para el pueblo pero sin el pueblo corresponde señorías al siglo dieciocho y desde entonces hasta ahora han

cosas en la vida pública y me da la impresión de que a algunos de ustedes les importa bien poco las actividades cotidianas de los habitantes de esa parte del territorio y tampoco les importan las necesidades de uso del territorio por parte de otras administraciones parodiando a algún personaje de una conocida película algunos podrían hacer suya la frase de mío el territorio es mío

apropiando del territorio al margen de las leyes que regulan la política territorial además

las herramientas que utilizan los demás y con ello aumentar la sensación de frustración ayudándose para ello si es necesario de medidas tan democráticas como dañar los bienes públicos o realizar ataques a las personas que representan asociaciones de concejo porque esto ha ocurrido en este caso señorías

puede producirse con independencia de que sea un área un espacio protegido parque natural o zona de especial conservación es exactamente igual no tienen ningún sentido señorías ya lo he dicho anteriormente

una parte del territorio municipal no le importa si se permite

para preservar el territorio de la comunidad autónoma del país vasco de los hipotéticos impactos parque natural todo el territorio autonómico algo que iría muy en la línea de aquellos

euskadi en una especie de reserva india señora rojo la verdad es que

más respetuosa con toda lo acontecido en este asunto pero me veo en la obligación de recordarle que hasta ayer a las dieciséis

su postura no era la que va a suscribir el día de hoy no no era la misma

defiendo una iniciativa para censurar para condenar para criticar la presencia

en el inicio y en el cierre del día de san sebastián y para que estos hechos no puedan volver a suceder en el futuro este año también hemos podido asistir a cómo se ha permitido la presencia de familiares de presos de eta exhibiendo sus fotos en el escenario principal

del día grande de la ciudad este año también se ha permitido la iconografía del abertzalismo radical y violento en el escenario principal de la plaza de la constitución de san sebastián con motivo del día de la ciudad

el gobierno municipal y el alcalde de la ciudad han permitido la exhibición de imágenes de presos de la banda terrorista eta así como la exhibición de una pancarta gigante en favor del acercamiento de estos presos a euskadi en la fachada de la biblioteca municipal este año también los donostiarras han tenido que soportar hemos tenido que soportar la propaganda del abertzalismo violento que no condena en la plaza de la constitución de san sebastián y en sus alrededores hablamos de hechos inaceptables hablamos de los presos de eta y de la propia eta

noventa y cinco en la propia ciudad de san sebastián no podemos no estamos dispuestos a aceptar año

y del gobierno municipal ante estos hechos repugnantes por lo que pedimos que el parlamento vasco se pronuncie porque además tales hechos afectan al conjunto

vasca por esto hemos propuesto esta iniciativa en la que proponemos que el parlamento vasco censure la actitud inaceptable del gobierno municipal de san sebastián y del alcalde

la exhibición de pancartas y propaganda favorable a los presos de eta banda terrorista que ha asesinado a centenares de ciudadanos en el conjunto de españa

personas en la propia ciudad de san sebastián queremos que este parlamento inste al

a impedir tales hechos o hechos semejantes en el futuro y que inste al resto de instituciones vascas y se comprometa él mismo a defender la memoria y la dignidad del terrorismo queremos que este parlamento inste también al gobierno vasco y al departamento de seguridad a que en el caso de que se mantenga la pasividad del ayuntamiento de san sebastián en la retirada de simbología favorable a los presos etarras durante la celebración del día de san sebastián intervenga para impedir dicha simbología

la memoria de los asesinados por eta y la dignidad de las víctimas del terrorismo y de la propia sociedad democrática no queremos volver a soportar estos hechos y tener que lamentarnos después sencillamente no queremos que vuelvan a ocurrir estamos ya hartos porque

lo mismo especialmente en los últimos años y años atrás también y estamos hartos de tener que ver lo que vemos y después tener únicamente que

actúen y que impidan que hechos tan repugnantes como los que año

no puedan volver a producirse más y por lo tanto queremos también dirigirnos al propio gobierno vasco al propio departamento de seguridad para que impida tales hechos

que no se permitan que se impidan y queremos obviamente que la fiesta

que no se ocupe el espacio público con símbolos proetarras que ofenden a la mayoría de la sociedad que no nos produzca vergüenza y asco a esas celebraciones o verlas por la televisión que no se produzca nuevamente este espectáculo lamentable y perfectamente orquestado y permitido

por el propio gobierno municipal ya digo año tenemos que soportar esto y yo creo que las instituciones algo tendrán que decir algo tendrán que decir creo que es algo que lo entiende todo el mundo simbología proetarra en las fiestas de san sebastián impedirlo o no hay una mayoría de grupos parlamentarios que quieren impedirlo sí o no creo que nuestra iniciativa es clara y concreta hay dos grupos que no han presentado enmienda y que creo que van a apoyarla la enmienda del grupo nacionalistas vascos es tan light como acostumbra

imposible poder defenderla nobasta con decir que criticamos la utilización sectaria de las calles sino que hay que decir mucho más que eso hay que decir que se trata de una ocupación

de la sociedad democrática hay que decir que nos comprometemos a impedir que estos hechos vuelvan a suceder

en la equidistancia señores del partido nacionalista vasco no se puede estar en esa posición o se está con la sociedad democrática o se está con los que insultan a la sociedad democrática a mí me hubiera gustado ciertamente que hubiéramos podido llegar a un acuerdo para decir dos o tres cosas sencillas para decir que estamos en contra de que estos hechos se reproduzcan y para decir y exigir tanto al gobierno municipal como al gobierno vasco el departamento de seguridad que se mojen y que impidan

puedan volver a ocurrir efectivamente no ha sido posible porque el partido nacionalista vasco no quiere pactar con upyd una transaccional que pudiera recoger esos mandatos a las diferentes instituciones desde luego

ya les digo señores del partido nacionalista vasco a la espera de lo que puedan decir

muchísimos votantes del partido nacionalista vasco en concreto en la ciudad de san sebastián no entenderán que ustedes no vayan a votar a favor de esta iniciativa pero en fin también vamos a escucharles a ver qué es exactamente lo que proponen y lo que dicen aunque en todo caso lo importante son los hechos y no las palabras

eskerrik asko presidente andrea es que no cabe duda de que además de aficionada a las soflamas nacionalistas como

el día pasado soy una light señor maneiro totalmente

el próximo año lo defenderemos con nuestra presencia en el pleno del ayuntamiento hoy lo llevamos al parlamento

pero sí parece claro que upyd de alguna manera ha querido comenzar la campaña electoral municipal

herriko festak batzuen alde pribatizatzen jardutea es una visión sectaria de la realidad el no reconocimiento de que hay otros que opinan otra cosa

ocupar el espacio público de forma sectaria o que no coinciden con los planteamientos de fondo de la izquierda abertzale en realidad

es una cuestión de respeto es una cuestión de cultura política no es que consideremos que hoy en día la cuestión es peor que nunca

en años anteriores pero sí sabemos que la democracia tiene distintos componentes y que uno de los principales componentes de la democracia es el respeto hacia los demás

y que es conveniente reconocer que el ámbito público es de todos y por ser de todos no es de nadie y que desde luego no puede ser utilizado de manera privativa ni abusiva

la propuesta del señor maneiro la hemos enmendado nos parece que no somos nadie para andar gaitzesten

fundamentalmente la de compartir una reflexión en esta cámara y fundamentalmente también con ustedes miren

yo creo que todos podríamos llegar casi todos al menos podríamos llegar a un punto de encuentro y es que nuestro país nuestra sociedad ha estado machacada

al menos tres y me circunscribo al periodo democrático

bombardeada continuamente por violencia por insultos por agresiones por desencuentros por espacios

por espacios festivos teñidos y manchados

borroka eta jaia por espacios festivos vedados también a muchos que no solo no compartían el borroka eta jaia sino que no eran de la cuerda de aquellos que querían extender el borroka eta jaia

en la que la violencia ha dejado una cosa fundamentalmente y ha sido sangre dolor familias destrozadas vidas perdidas

una sociedad extraordinariamente politizada en el sentido

en la que a todo a casi cada hecho social

tienen una etiqueta política una sociedad

que muchas veces nos cuesta afrontar reflexiones desde la serenidad

es que incluso el espacio público ese que efectivamente no tiene que tener color o no debe de tener color en todo caso debe permitir la manifestación de cualquier color ha estado mediatizado ha estado violado ha estado absolutamente condicionado

y todas sus consecuencias y todas sus derivadas y la realidad también es que en ese escenario que hemos vivido quenos suena tan viejo

la realidad también es que no todos podemos utilizar el espacio público incluso no todos podríamos alterar el espacio público igual que lo alteran estos señores

porque si bien es cierto que se puede poner en cualquier fiesta de cualquier plaza de euskadi un cartel que ponga amnistía o gora eta o cualquier otra cosa no se puede poner

automáticamente un signo de enfermedad es ese también

de prepotencia miren esto no se trata de cuantificar cuántos son más o cuántos son menos los que quieren que haya pancartas en este caso concreto

porque yo creo que es una cuenta que no admitiría ni un debate obviamente la inmensa mayoría de la población vasca quiere disfrutar las fiestas sin color político y desde luego sin tensión de ningún tipo sin soflamas y sin que lo bombardeen con ningún tipo de mensaje político eso es

la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tipo de sociedad queremos construir de ahora en adelante ya sabemos quién la ha tensionado ya sabemos quién ha aprovechado cualquier manifestación cívica y en este caso festiva para intentar hacer política y también en la peor de sus acepciones la pregunta es vamos

esté politizada en la peor de sus acepciones que ni tan siquiera las fiestas las fiestas patronales de un municipio en este caso de donostia se puedan vivir con ausencia total de esa política que tanto ha manchado

en esas formar y en esos usos se han quedado muy viejunos muy anclados en el pasado

machacona y torticera también de la utilización privativa

que impide que estas cosas sucedan se han quedado anclados en ese mensaje tan viejo y tan caduco se han quedado muy anclados en esa visión de esa euskadi enfrentada en esa visión de esa euskadi politizada en compartimentos estancos

o hacen algo ya o el tiempo también corre en su contra y no tenemos porque soportar que el espacio público sean fiestas

sea utilizado torticeramente sea violentado por nadie tampoco por ustedes

si alguien no puede que ya está bien son ustedes por lo tanto además

de alguna herramienta nos dota y somos quienes defendemos el estado de derecho con sus imperfecciones

podemos utilizar esas herramientas hay una responsabilidad política de primer orden en todo lo que ha sucedido en euskadi a lo largo de estos años y que siguen sucediendo hoy

ya basta de violentar el espacio público ya basta de tensionar a la sociedad vasca ya basta de utilizar esas soflamas

donde quieran pero en espacios privados suyos decórenlos como les dé la gana

con más optimismo ya nos han machacado bastante con esas soflamas y con el borroka eta jaia ya vale

señorías yo quiero hoy invitarles a que hagamos memoria a que recordemos que

las fiestas los acontecimientos deportivos y culturales de euskadi en su gran mayoría y en muchos casos con absoluta impunidad eran aprovechados por los radicales abertzales para hacer propaganda de eta para colocar

o pancartas que hacían homenajes o recordaban a los presos condenados por terrorismo ofendiendo la memoria y la dignidad de las víctimas

en las fiestas o también en algunos acontecimientos deportivos o culturales se convocaban manifestaciones que luego acababan en muchos casos destrozando la ciudad o el pueblo del que se trataba

ilegales les invito a que recordemos que durante muchos años en euskadi había espacios de impunidad donde

espacios públicos o recintos festivos

no entraba con la excusa de que había que evitar

les invito a que recordemos también que una gran parte de la ciudadanía soportaba esta ocupación e instrumentalización

o mirando para otro lado especialmente cuando veían alguno de sus responsables políticos institucionales que no tomaba ninguna decisión

que esto se hiciera quiero que recordemos que existían muros de la vergüenza como en mondragón y otros muchos pueblos de euskadi donde permanecían por muchísimo tiempo con absoluta impunidad porque no se retiraban quiero que recordemos que en euskadi

que usaba e instrumentalizaba los servicios públicos para hacer apología del terrorismo defender sus posiciones o insultar la memoria y dignidad de las víctimas y que tuvo que pasar mucho tiempo

políticas de firmeza democrática y tolerancia cero políticas que se demostraron eficaces

y políticas también para desde la política combatir a todos aquellos que querían usar las instituciones para

a las actividades terroristas y se pusieron en marcha también medidas para que aquellos que desde la política querían amparar y justificar el terrorismo

y fueran ilegalizados y hay que recordar que algunos con muchas responsabilidades institucionales se opusieron a estas medidas decían que no eran homologables desde un punto de vista democrático después

sino que eran absolutamente necesarias para defender el estado de derecho y luchar contra el terrorismo después juntos

para acabar con los espacios de impunidad fuimos impulsando que la policía y la justicia intervinieran para evitar que se ocuparan

estuviera vetado a la intervención de la policía había que hacerlo con prudencia con profesionalidad pero se hizo y se demostró que era posible intervenir

la instrumentalización la utilización de los espacios públicos fuimos alcanzando acuerdos con todas las administraciones no sin reticencias me remito a las hemerotecas

pusieran medios y recursos en gran parte incluso financiados por el gobierno vasco para retirar pancartas carteles que o bien vulneraban la ley hacían apología del terrorismo o propaganda de presos etarras condenados por terrorismo que ofendían la memoria

en que pusimos en marcha medidas para atender más si cabe a las víctimas del terrorismo y también quiero decirlo

para atender y reconocer a otras víctimas

la que nos permitió acabar con las actividades terroristas de eta y que el mundo que le daba amparo y justificación

entendieran que solo podían hacer política asumiendo las reglas de juego que nos habíamos dado

vivimos un tiempo nuevo sí y todos tenemos que felicitarnos por la situación en la que estamos pero desgraciadamente

que sigue instalados en comportamientos del pasado sigue habiendo intentos como el que estamos debatiendo hoy y otros muchos en euskadi de instrumentalizar las fiestas acontecimientos deportivos y culturales para plantear reivindicaciones particulares exhibir carteles de eta que ofenden la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo

les he emplazado a hacer memoria les he emplazado a hacer memoria para que

para combatir a ese mundo con todos los instrumentos del estado de derecho y todos juntos allí donde sea necesario porque si algo ha demostrado el pasado es que

la ambigüedad la falta de exigencia no llamar a las cosas por su nombre la falta de firmeza democrática no son útiles para combatir estos comportamientos por lo tanto es necesario mantener siempre la guardia alta

hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esto ocurra y mire la diferencia entre el actual alcalde de san sebastián

alcalde odón elorza es que este alcalde seguramente

aplaude que está encantado y probablemente incluso colabora a que se pongan esas pancartas

otra cosa es que se pusieran y que después no se hubieran adoptado los medios para intentar evitarlo cosa que también después fuimos perfeccionando

para recordarle al gobierno y al lehendakari que aprenda del pasado que hay políticas que son eficaces para evitar estas cosas y otras que no lo son que hay que mantener la exigencia y la firmeza poner todos los medios a nuestro alcance para evitar que esto ocurra porque si no

permitir que se pongan unos carteles y después algunos pueden volver otra vez a las andadas

reclama que todos nos comprometamos a que esto no ocurra o que al menos pongamos todos los medios para que no ocurra sí desde la proporcionalidad

pero también desde una posición política imprescindible las cosas se ganan en la sociedad cuando hay criterios básicos y firmes cuando hay principios éticos que uno no renuncia a defender cuando uno no mira para el otro lado

quiero también una vez más referirme a la que no ha sido enmienda admitida pero a la que seguramente el portavoz

va a hacer referencia porque en esa enmienda se hablaba de presos vascos y yo una vez más tengo que recordarle

pero no están en la cárcel por ser presos vascos están en la cárcel por ser presos condenados por delitos terroristas y también recordarle que

volverán a su casa no por amnistías ni soluciones colectivas

que tienen que recorrer lo previsto en nuestra legislación vigente cuando ustedes le permitan a esos presos a hacer lo mismo que hacen ustedes porque ustedes

una legalidad vigente que parece ya no solo no animan

recorrerla por eso para abordar cuestiones como las que hoy estamos abordando era necesario hacer historia

tratar estas cosas con sentido común con profesionalidad con firmeza

lelo bat etortzen zitzaidan burura paredes mudas como en la dictadura eso parece ser el lema que

en esa pancarta grande en un pueblo grande de euskal herria aparecía una reclamación concreta etxera una reclamación amplia sentida dentro de esta sociedad

cuál es el acceso a su libertad cuál es el derecho a acceder

maneiro parece querer presentarlo como propaganda favorable a los presos de eta y por tanto propaganda favorable a eta y además una propaganda que humilla a las víctimas una postura a la cual el señor sémper se

el señor ares se nos va a otra galaxia ya mezclando absolutamente cualquier otra cosa parece que la interpretación que hacen de esta pancarta de este lema de la pancarta no entraría en ese tipo penal en esas herramientas de las que dice el señor sémper que se ha dotado el estado

dotar a este hecho del grado de gravedad del grado de escándalo suficiente

reprimir con esas herramientas con esa fuerza con esa violencia del estado absolutamente desproporcionada con la cual los tres grupos políticos estos suele dar respuesta

todos los problemas tipos extensos tipos expandidos el de apología o el de enaltecimiento que parece que no son suficientes

denominada caza de las fotografías de la cual se jacta el señor ares el justiciero

y convertirla en una especie de nueva y renovada caza del cartel

de la pancarta o caza tal vez de la pegatina una dinámica de tensionamiento social que considerábamos

parece ahora se quiere volver a resucitar algo lógico desde la crónica irresponsabilidad del proponente de quienes dicen que van a apoyar su posición

que van a mostrar a esta iniciativa decía la señora portavoz del grupo nacionalistas vascos que estos hechos vienen sucediéndose

y es cierto y por eso proponemos que se impidan en el futuro que no se vuelvan a producir más y es cierto que no lo hemos propuesto en otras ocasiones

nos acusa de estar obsesionados con estos temas no no lo hemos propuesto en estos seis años y seguramente tendríamos que haberlo propuesto el trabajo parlamentario se nos acumula y no llegamos a todo pero desde luego después de tantos años soportando tantas pancartas insultantes al conjunto de la ciudadanía

esta iniciativa o una iniciativa semejante y es lo que nosotros hemos hecho para defender la dignidad de la sociedad para defender a las víctimas del terrorismo porque estamos hartos también militantes suyos también votantes suyos del partido nacionalista vasco hartos de tener que soportar

sino que estamos hablando de pancartas que insultan a la sociedad pancartas que reivindican a una banda terrorista y esto es absolutamente inaceptable

últimamente no puede acudir y algunos de los que están por aquí no han podido acudir sencillamente nunca pero

como parte del paisaje y creo que siempre hay que ir un poco más allá en la defensa de la libertad ciudadana

esta propuesta va en esa dirección que no admitamos como normales hechos que no son normales

inaceptable a la sociedad democrática no quiero hablar de los malos sino de los buenos sobre todo ya lo dijo gandhi

y no admito no puedo admitir no puedo comprender

en la defensa de estas cuestiones no podemos mirar para otro lado no podemos aceptar como normal lo que no es normal por eso insisto y hago un llamamiento al partido nacionalista vasco

e impidan que estos hechos vuelvan otra vez a ocurrir decía la portavoz nacionalista que no somos nadie

y aquí está representada la voluntad popular qué es esto de que nosotros no somos nadie somos los representantes de los ciudadanos no estamos hablando de un tema municipal no estamos pidiendo al ayuntamiento de san sebastián que

y pienso que este parlamento no solamente puede sino que debe decirlo debe decírselo al ayuntamiento de san sebastián debe decírselo al alcalde que esto no puede permitirse y que tiene que impedirlo no solamente no tiene que facilitarlo sino que tiene que impedirlo y creo también que el gobierno vasco y el departamento de seguridad

no puedan volver a ocurrir no hablamos de que no puedan expresarse ideas políticas democráticas sino de que se persigan y se impidan las expresiones violentas de esto es de lo que estamos hablando de impedir que la simbología

pueda campar a sus anchas en las diferentes calles y plazas de euskadi de esto se imaginan la presencia de fotos de violadores en las calles vascas se imaginan ustedes esvásticas en las calles en las plazas de euskadi sería absolutamente inaceptable sería inadmisible no se podría admitir ni un segundo y habría que suprimirlas esto es lo que nosotros estamos planteando y por lo tanto en fin pedimos al grupo nacionalista que vote a favor de esta iniciativa y al lehendakari que lo reivindique también en fin el portavoz

de expresión libertad de expresión resulta ahora que es reivindicar a una banda terrorista que ha asesinado a centenares de personas y a noventa y cinco en la ciudad de san sebastián esto no es libertad de expresión esto es insultar a las víctimas del terrorismo y al conjunto de la sociedad

que durante décadas no han permitido la libertad de expresión pretenden darnos lecciones al resto

ustedes hacemos la prueba ponemos una pancarta ese día o esa noche en la ciudad de san sebastián o en esa misma plaza que dijera algo así como viva la guardia civil a ver qué es exactamente lo que ocurriría

la suprimiría y eso que es una institución democrática

esa es la realidad eso es lo que ustedes entienden por libertad de expresión

no podemos admitir que ustedes vean como normal que se sigan colocando pancartas proetarras

de defensa de la actividad de eta esto es lo que estamos criticando y desde luego no vemos ni medio normal que el partido nacionalista vasco otra vez señor lehendakari se mantenga

pero es que es necesario todavía a día de hoy en el año dos mil quince presentar este tipo de iniciativas dejen de estar permanentemente en la equidistancia acompañen a la sociedad democrática y a las víctimas del terrorismo señor lehendakari voten a favor de esta iniciativa

el señor ares ha venido a hacernos una autorreivindicación de su política

consejero de interior fue nombrado el año dos mil nueve y es verdad que en los san sebastianes del año dos mil nueve no lo era no era todavía consejero de interior también es verdad que hablando de donosti

el ayuntamiento de san sebastián es verdad que ir a la hemeroteca hoy en día resulta fácil

y te salen montones de entradas desde luego no voy a hacer referencia a todas pero año dos mil nueve cuando el señor ares todavía no era consejero el país decía

la de palestina lucía en el número setenta y dos un anagrama de eta de varios metros de largo colgaba debajo del ciento catorce

y hay unas palabras de múgica

efectivamente víctima y por tanto especialmente sensible supongo con todos estos temas lógicamente

esto era el ayuntamiento del psoe de donosti y el partido socialiste gobernaba y el señor ares era consejero

en lakua efectivamente ha dicho que

todos los demás que parece que mientras permitían

no voy a entrar en esa disquisición desconozco cuáles eran las gestiones del señor odón elorza lo que conozco es lo que he visto en las calles de donosti lo que he leído en la hemeroteca

sino denis itxaso estaba en ese ayuntamiento que es candidato a la diputación de gipuzkoa o estaba el propio señor gasco sino me equivoco

una reclamación sentida por esta sociedad podrá serlo

en todo caso difícilmente será nada ninguna reclamación sentida por el todo de una sociedad será sentida por una parte minoritaria mayoritaria en todo caso importante porque todos los somos de una sociedad y hablo de cualquier reclamación pero tomar la parte de uno mismo por el todo eso exactamente eso responde a la pregunta que el señor arzuaga hacía de lo qué es ser sectario eso es

está en el poder en donosti existe una ordenanza como en muchos sitios esas que dicen que no se pueden colgar carteles ni pancartas

no se puede poner y punto qué pasa con bildu

pues pasa que es muy permisiva con la necesidad de la propia

de expresar su libertad de expresión valga la redundancia en toda la parte vieja de donosti

expedientes sancionadores en aplicación de esa ordenanza a otros que quiénes son otros caritas otro atzegi

entidades y personas han sido no sé si al final multadas habida cuenta

pero desde luego si puestas en el ojo de aplicación de esa ordenanza sancionatoria mientras al mismo tiempo y durante todo el tiempo la parte vieja de donosti está pletórica de libertad de expresión de quién

eso es ser sectario y no estamos para nada hablando de apología estamos hablando de respeto y de simplemente ver la realidad en la parte que nos gusta

o que no nos gusta o que no es indiferente y estamos hablando básicamente de respeto y de no utilizar el espacio público para imponer mensajes que serán compartidos por algunos pero que difícilmente por no decir rayando lo imposible absoluto

eso es ser sectario y las dobles varas de medir acaban aburriendo eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga

sí si me permite señor arzuaga vamos a profundizar un poquito más en el debate sobre la libertad de expresión esa frase a la que usted se agarraba paredes mudas como la dictadura

si usted en su domicilio particular encontrará mañana tras mañana semana tras semana pintadas por ejemplo en la que pone arzuaga en el próximo en la lista arzuaga con un punto de mira arzuaga te vamos a matar arzuaga fuera de euskadi

continuamente durante años a usted le parecía un ejercicio de libertad de expresión

le parecía un ejercicio de libertad de expresión pues mire no

ah no no le parece un acto fascista que alguien pudiera pintar en la puerta de su casa arzuaga te vamos a matar

cómo calibramos unos y otros o qué interpretamos qué contenido político le damos unos y otros a

las sociedades democráticas son sociedades plurales que

de convivencia de qué cosas se pueden hacer qué cosas no se pueden hacer qué cosas son punibles qué cosas no lo son

las manifestaciones de esa pluralidad para que todo el mundo tenga

y no sea la ley del más fuerte o la ley del más bestia en euskadi durante demasiados años durante demasiadas décadas ha imperado la ley del más bestia aquel que está dispuesto a descerrajar un tiro en la nuca por pensar de una manera diferente ha imperado la ley del más bestia consistente

y el que se oponía era agredido lo machacaban

la ley del más bestia lamentablemente en un estado de derecho moderno como es el nuestro y una tierra moderna

ha imperado la ley del más bestia protegido y defendido y justificada políticamente por estos señores a los cuales o abrirían un debate sobre si arzuaga asesino o borja sémper asesino en la puerta de su casa

o no esta es la base fundamental

que no son aceptables que amenazar a alguien porque piense diferente que hacerle una pintada utilizar un espacio público para una reivindicación política particular no es aceptable porque supone vulnerar supone violentar la convivencia

burda e intolerable lo que es de todos la plaza pública el espacio en el que todos tenemos que tener la misma libertad para poder manifestarnos dentro del orden

y a ustedes esas reglas de convivencia no les valen no les importan el propio ayuntamiento de san sebastián se lo han recordado antes yo se lo voy a recordar también un poco antes

que dice cómo los donostiarras o en esa ciudad qué se tolera y que no

como se han pasado otras muchas cosas a lo largo de estas décadas

la pregunta que nos tenemos que hacer los demás es estamos dispuestos a seguir tolerando esa vulneración sistemática de las reglas de convivencia de las que nos hemos dotado estoy absolutamente convencido que no no nos tiremos los trastos a la cabeza entre nosotros

porque engordan quienes no creen en las reglas de convivencia de las que nos hemos dotado en el pasado unos y otros actuamos de maneras diferentes y probablemente algunos se equivocaron más y otros acertaron más da igual yo creo que ahora estamos para construir nosotros defendemos que ahora estamos para construir una euskadi diferente infinitamente mejor de lo que ha sido la euskadi

pero nosotros no vivamos mirándoles de reojo a ver qué hacen o qué no dejan de hacer e impongamos las reglas de las que nos hemos dotado que son reglas de convivencia democráticas

solo podremos superar esa euskadi de vergüenza en la que el asesinato y el insulto y las pintadas y las pancartas se aceptaban casi con naturalidad si los demás

estos señores se sumarán o no pero dependerá de ellos dependerá en exclusiva de ellos intentar flexibilizarnos flexibilizar esas normas tirarnos los trastos a la cabeza entre nosotros no nos servirá de nada

lo que es intolerable es que hoy en el año dos mil quince

en la trinchera y no vean que euskadi ha cambiado y no precisamente gracias a ustedes y no precisamente por ustedes muchas gracias

a nadie he hecho historia y lo he dicho para que aprendamos del pasado para que no cometamos los errores que cometimos en el pasado unos y otros

para que entendamos que la forma de combatir comportamientos incívicos

es hacerlo defendiendo posiciones de firmeza democrática valores éticos y democráticos profundos abandonar la idea

con prudencia cuando se puede con rigor con criterio profesional pero hay que intervenir y durante mucho tiempo y usted lo sabe como yo

camparan a sus anchas y por eso no vale por ejemplo su enmienda porque no vale solo con censurar hay que comprometerse

hay que tomar la decisión de que uno se opone al frente del rechazo y la repulsa

en todas las instituciones donde se gobierna o donde uno está representado para evitar que eso ocurra es a lo que yo le emplazo a usted y a su grupo y al gobierno a tomar medidas siempre que sea posible pero a tomarlas para evitar que la instrumentalización y la utilización de los espacios públicos siga

mire no solamente había carteles que reivindicaban presos a casa había carteles y pancartas con fotos de presos

no lo dice este parlamentario lo ha dicho la justicia es hacer homenaje o reivindicar a los presos terroristas de eta y quien tiene la responsabilidad de velar porque no se ofenda la memoria y la dignidad de las víctimas tiene que actuar

ha hecho referencia a que cuando yo no era consejero también había pancartas y además ha citado una expresa una pancarta que hacía apología del terrorismo y de eta pues sabe quien tenía que haber tomado decisiones para que eso no ocurriera el departamento de interior

quien vela por el cumplimiento de la ley quien vela por el cumplimiento de la ley

la dignidad y la memoria de las víctimas para que se cumpla la ley

el gobierno vasco y yo no he

mire lo que pasó cuando yo era consejero es que todos los propietarios de balcones en esa plaza donde se celebraba la tamborrada recibían una nota diciéndoles que les hacíamos responsables

ofender a las víctimas del terrorismo o vulnerar la ley y eso es una forma de actuar que antes no se hizo y que yo reclamo que se haga porque es la forma de hacerlo con prudencia así como otras muchas medidas tomar medidas por ejemplo para que los presos

en las fiestas porque esa es responsabilidad de todos y mire

intentar quitar todas las pancartas todos los carteles con los medios que tenía el ayuntamiento a su alcance por lo tanto cada uno

también le recuerdo que por ejemplo cuando yo era consejero

se hicieron en el momento más adecuado y no hubo prácticamente incidentes

de dejar hacer con la excusa de no crear incidentes hay que hacerlo cuando es posible

pero hay que hacerlo hay que tener la voluntad la valentía de hacerlo

el problema no son paredes mudas el problema son paredes limpias

y no me haga trampa en la tamborrada de san sebastián no solamente había carteles

no había carteles

con fotos de presos terroristas condenados por terrorismo y usted sabe como yo

y espacios públicos y por lo tanto también ahí

y mire usted puede seguir instalado en esa campaña

yo le ruego que no me dé lecciones porque mire lo que nos diferencia a muchos de ustedes y a otros muchos incluido a mí es que cuando eta asesinaba cuando eta cometía atentados nosotros salíamos a las calles para mostrar nuestro rechazo y nuestra repulsa para reivindicar democracia

en algunos casos incluso con algunos de ustedes había otros que gritaban eta mátalos y desgraciadamente después hubo momentos en que eta mató a algunos de los que estaban enfrente por lo tanto no me dé lecciones yo

pero lecciones ninguna absolutamente ninguna y

reitero ustedes que están tan cómodos pisando moqueta porque han aceptado la legalidad para hacer política permitan animen

para que puedan acogerse a las reglas de juego que nos hemos dado

y efectivamente poder volver a casa lo antes posible con políticas eficaces

cómo le gusta señor ares había fotos de presos

torquemada dos punto cero anatema ante las fotos de los presos

usted pueda mandar a actuar para que usted pueda amenazar a los vecinos para que usted demande más violencia la suya en este

la conciencia democrática la dignidad expresiones inaceptables bien corresponde al ámbito de lo

organización terrorista arzuaga te vamos a matar no distinguimos lo que es debate político de lo que es actuación

ponía etxera en la pancarta que hoy el señor maneiro nos trae ponía etxera

porque parece ser que ustedes no ven la diferencia arrancan se

con el exceso verbal y se termina con el exceso fáctico como el señor ares bien nos demuestra parece que han descubierto esta reivindicación porque había una gran pancarta en donostia parece que los que la pusieron han cumplido su objetivo

que era poder comunicar esa situación cuál es el problema que se veía mucho la pancarta qué le hacía tan especial que era en donostia

televisión y que después apareciera en la televisión cuál es el problema que tenía mucho impacto parece que hay que dar razón a los que la pusieron porque es cierto que ha tenido impacto y cumplieron su objetivo comunicativo

arriskua en cierta manera entiendo que no lo entiendan activismo militancia trabajo o lucha política pueblo reivindicativo

de las acepciones en el mejor de los términos pero no solo de la izquierda abertzale

que nosotros impulsamos porque creemos que ese es el modelo que a ustedes menos les conviene que esas reivindicaciones que esa política que ese conflicto que está en la sociedad

de expresión es por eso que termino como he empezado existen paredes mudas como en la dictadura y ante esa situación euskal herria bilduk esaten du

presidenta eh bildu nos trae a debate el

atribuido a confebask pero que confebask no asume como propio en este parlamento se han debatido borradores que

supuestamente el gobierno va a llevar al consejo de ministros

anteproyectos de ley pendientes todavía de debate en este parlamento se han debatido supuestas declaraciones realizadas por distintos

en este parlamento incluso se ha debatido sobre supuestos pensamientos que ha tenido algún consejero mientras dormía y finalmente debatimos hoy un documento que nadie admite como propio y que nadie defiende como tenemos tiempo

vamos a dedicarle también unos minutos a esta cuestión euskadi no tiene graves problemas al fin y al cabo por lo tanto sobre un documento que nadie reivindica en este documento supuesto supuestamente

como podrían ser iniciativas o actividades o posicionamientos en materia fiscal sobre cláusulas sociales o en relación

entre otras según este supuesto documento dichas actividades se alejarían de las actividades propias de un sindicato y por tanto y como consecuencia de ello

del registro de organizaciones sindicales ya digo voy a entrar en el debate aunque

ante esta propuesta real o imaginada cabe recordar

el artículo siete de la constitución española que sí que existe atribuye a los sindicatos y a las asociaciones empresariales la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios de ello podríamos deducir que el papel de los sindicatos y de las asociaciones empresariales se limitaría a la defensa de intereses profesionales

podría haber vulnerado la legalidad vigente al haber extralimitado supuestamente su papel constitucional desde el momento en que se ha venido posicionando sobre distintos asuntos públicos

cabe sin embargo una interpretación más amplia del artículo siete de la constitución atendiendo precisamente al restante texto constitucional y valorando

la democracia o la participación política de los ciudadanos atendida en su conjunto podemos concluir que la constitución no limita la función de los sindicatos y asociaciones empresariales a la protección de sus intereses económicos sino que extiende su labor a la promoción de los intereses sociales

amplia de la constitución española les permitiría por tanto posicionarse sobre todas las materias imaginables tal como habitualmente hacen hacen y hacemos por cierto en sentencia del tribunal constitucional dieciocho barra mil novecientos ochenta y cuatro de siete de febrero el tribunal constitucional señala que los sindicatos son instituciones del sistema democrático en repetidas sentencias el tribunal constitucional ha manifestado que los sindicatos desempeñan tanto por el reconocimiento expreso de la constitución

de los tratados internacionales suscritos por españa en la materia una función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores

es decir a fecha de hoy viernes todos tenemos claro cuáles son las funciones que cumplen las asociaciones empresariales y las organizaciones sindicales

un papel imprescindible siempre que sean organizaciones democráticas ambas cumplen un papel imprescindible

estrategia dicho esto ya digo que confebask negó la autoría de dicho documento y dijo además que ese documento no reflejaba el sentir de la patronal

que la patronal defiende y cree en el papel que en una sociedad democrática corresponde desempeñar a los sindicatos y a las organizaciones empresariales esto es lo que dijo y siguió diciendo que la inclusión en estatutos del diálogo social y la participación institucional

de incorporarse a estos en los términos que consideren oportunos sin que en ningún caso el grado de implicación pueda llevar aparejada

del registro esto es lo que dijo por nuestra parte creemos en el papel de los sindicatos y en el papel de las asociaciones empresariales en particular la lucha sindical ha sido históricamente

como decía antes independientemente de las estrategias que unos sindicatos u otros decidan seguir en un momento determinado en fin esto es lo que nosotros hemos querido plasmar

proponíamos que este parlamento reconozca la dimensión sociolaboral y sociopolítica de las organizaciones empresariales y sindicales

de los medios típicos de acción que le son propios y las diferencias de otras asociaciones en función

en ningún caso que pueda excluirse del registro de organizaciones empresariales o sindicales a aquellas que no lleven a cabo el ejercicio

constaba de dos puntos que son exactamente iguales

enmienda del partido nacionalista vasco también están recogidos en la transaccional que ambos grupos no han firmado no he firmado la transaccional
no hemos podido físicamente hacerlo pero estamos de acuerdo con lo que ahí se propone y votaremos a favor de ese texto gracias eskerrik asko maneiro jauna

a nosotros nos parece que este debate no el debate el propósito inicial del debate es artificial no lo siguiente artificioso muy artificioso pero esto tuvimos ocasión de decir en sede parlamentaria a los proponentes de este tema

se dijo entre otras cosas porque ellos no participan de este debate

pareciéndonos esto nosotros tenemos que tomar en serio porque un grupo parlamentario en este caso eh bildu trae este tema aquí y vamos a tomarnos en serio

ni este ni ningún otro nosotros lo rehuimos ni nos resulta tampoco no nos resulta incómodo salvo por el hecho de que tenemos que hacer también una

sindical cosa que a este parlamentario desde luego le pesa no es propósito censurar actividades sindicales que libremente eligen pero el hecho de traerlo aquí en esta kalejira de un documento nos parece que realmente es

las cosas en los términos en los que están vamos a entrar en la parte que ustedes plantean la parte propositiva

entendida en sentido amplio bueno eso es un desiderátum la libertad sindical por lo menos regulada en la ley orgánica

define cuál es el ámbito de esa libertad sindical la pregunta que yo le hago

proponen de carácter ilimitado va más allá de los medios típicos la negociación colectiva

no quiere decir que ahí se agote la actividad sindical no seré yo quien afirme tal cosa pero cuando ustedes plantean que pueden elegir libremente los medios quiero suponer que estos no incluyen la creación de somatenes o cosas semejantes es decir la ley ya define cuál es el ámbito

por otra parte la propia ley plantea los procedimientos para adquirir la personalidad jurídica es que no es confebask el que puede plantear eso por mucho que quiera o deje de quererlo es la propia ley la que plantea cómo se adquiere la personalidad jurídica y cuál es el control jurisdiccional cuando los estatutos puedan no ser

y eso está en la ley y desde luego hasta el momento no hemos visto cuestionamiento ni por parte de ustedes ni las centrales sindicales citadas que haya un cuestionamiento a la ley que garantiza el derecho

es verdad que este es un tema interesante porque

el sindicato más representativo y la mayor representatividad también está en el ordenamiento recogida como una facultad extra

cuál es el propósito que le lleva a auspiciar y a

ayer tuve ocasión de escuchar con atención además a su secretario general y me parecía de alto interés escucharle porque realmente muchas dudas y muchas incógnitas al menos yo tengo sobre cuál es el propósito de ela o qué es lo que quiere ser realmente

a la mesa de diálogo social no van porque ellos quieren hablar de política fiscal y se les dice que no esto fue lo primero que me llamó la atención porque yo creo que

y todo el mundo el debate sobre política fiscal no está acotado a ninguna élite ni a ningún grupo privilegiado el debate fiscal es permanente y concierne a toda la sociedad y especialmente cómo no a los sindicatos ahora bien hablar de política fiscal es una cosa

entre empresarios y sindicatos en materia de política fiscal

que los debates de política fiscal son opacos que las diputaciones

permiten que sea diáfano el debate sobre fiscalidad ustedes están en una y junto con nosotros algunos acuerdos en materia fiscal hemos llevado a cabo en gipuzkoa

no se habla en juntas de fiscalidad yo creo que sí en las de gipuzkoa y entiendo que en el resto otra cosa es que esos sindicatos no están presentes allí efectivamente si quieren pueden hacerlo pero tendrían que ser otra cosa distinta a un sindicato tendrían que ser una fuerza política obviamente por lo tanto qué quieren ser

es importante porque a fin de cuentas la actividad política

es una actividad que se puede ejercer más allá de lo que son las instituciones sí pero saber cuál es el alcance

de la actividad que uno puede desplegar y que puede realizar también es importante el ejercicio de esa

afecta a todos los sindicatos sea cual sea su representatividad pero es que resulta

tienen esa mayoría sindical por lo visto no deben de tener derecho a ejercer ese tipo de actividades en materia de negociación colectiva o de diálogo social como que no quién limita entonces el derecho de libertad sindical porque

a no ejercer esos derechos si no quieren o a no practicar esos ejercicios pero tratar de impedir que otros sindicatos lo lleven a cabo cuando la ley cuando el derecho de libertad sindical se lo permite me da la impresión de que eso sí es una clara delimitación del derecho de libertad sindical a otros sindicatos

y es que la ley tiene en cuenta la representatividad no habla de mayorías que se puedan formar en función de alianzas o de coyunturas sino sindicatos más representativos el primero es ela

el hecho de que no tengan alianzas de que no tengan unidad de acción sindical no quiere decir que el concepto de mayoría sindical se pueda imponer

de lo que sea menester pero ustedes aceptarían en un gobierno foral que las decisiones fiscales se acordaran por parte de los empresarios y de los sindicatos

tanto aberrante lo cual no quiere decir ni excluye el derecho a hacer sus aportaciones a plantear sus propuestas a analizar con criterio

todas las debilidades que tiene el sistema fiscal o las políticas fiscales actuales son cosas distintas nosotros nos parece haber traído esto aquí con toda esta confusión sobre la paternidad o no paternidad del documento

al síndrome del emperador que en el campo de la psicología se aplica un comportamiento infantil

es que realmente no se puede venir a decir en definitiva por muy alambicado que sea el discurso que esa mayoría sindical

o que la agenda política tiene que girar alrededor de lo que ellos planteen

bajo otra fórmula porque sea cierto o no lo que dice ese documento sea cierto o no la paternidad lo que está claro es que no es posible que el privilegio

que tienen los sindicatos por el hecho de serlo pueda servir para cuestiones extramuros de lo que es la actividad sindical entendiendo que este es un que hacer

no acotado porque todos los problemas y todas las cuestiones que afectan al cuerpo social son también motivo de interés para los sindicatos pero es que resulta que ellos no van al consejo económico y social vasco porque dicen que allí no se tratan los temas fiscales pero sí van al español porque allí sí se tratan bueno pues que digan abiertamente

porque es que la facultad de tratar los temas fiscales reside donde reside y es que eso en principio no lo cambiamos

acuerdos parlamentarios que digan otra cosa pero a día de hoy esto es así

se da la gran paradoja de que ela acude

no sé con cuánta posibilidad de influir en él pero no al de aquí

gai honekin el origen de tanta actividad preguntas interpelaciones comparecencias es un documento de alegaciones que supuestamente

con el borrador del real decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales y décimos supuestamente porque confebask ha negado su autoría

asunto concluido como decíamos también la semana pasada o hace diez días en la comisión lo mismo que décimos hoy aquí les trasmitimos a los representantes de ela y lab en la comparecencia ante la comisión

ambos sindicatos insistieron en dar credibilidad al documento de confebask a pesar de que la patronal no reconoce su autoría una vez más para nosotros este asunto está finalizado pero bildu

lo que supuestamente dijo confebask y que esta a su vez niega haber dicho o haber escrito agerraldian argi

dugu queremos que quede clarísimo

como no podía ser de otro modo además puesto que es un derecho fundamental y una de las piezas fundamentales del sistema de relaciones laborales propio de un estado social y democrático de derecho reconocemos la labor de los sindicatos

y de la mejora y en la mejora de sus condiciones de trabajo así como la soberanía de la que gozan para establecer su organización interna y límites de actuación

en la enmienda transaccional se pide a los poderes públicos que promuevan el derecho sindical

o dificulten su ejercicio y por último se rechaza el que se pueda excluir del registro de organizaciones empresariales y sindicales

de acción este último punto es el que en la supuesta alegación de confebask mayor malestar generaba a los sindicatos y por eso

que no estamos de acuerdo con ese artículo del borrador del decreto

muchas gracias señora presidenta pues por quinta vez en este parlamento vamos a hablar y debatir sobre un documento que no existe es decir sobre la nada bueno pues quinta vez porque

ciudadanos vascos nosotros no hemos hecho ninguna enmienda

a la proposición de bildu porque no vamos a entrar en el juego

todos creemos en la libertad sindical que es lo que propone al final bildu en el primer párrafo porque nadie ha puesto en cuestión

que gracias a dios no depende de bildu como ninguno de nuestros derechos fundamentales porque sino a lo mejor no nos quedaba ninguno ni depende de este parlamento

está recogida en el artículo veintiocho de la constitución en el punto uno

y luego consagrado en la ley orgánica once barra ochenta y cinco que se llama de libertad sindical y digo que se llama de libertad sindical

y ustedes señores de bildu nos están diciendo que es que con unas alegaciones a un decreto se puede cargar todo esto por lo tanto está en riesgo supuestamente la libertad sindical y como todos sabemos que es mentira incluido ustedes

claro la pregunta que hay que hacerse es para qué estamos aquí hoy hablando de esto

esa misma ley en el artículo trece de esa ley dice que cualquier trabajador o sindicato

en el proceso de apropiación jurisdiccional de los derechos fundamentales porque así está contemplado en la constitución y a día de hoy nadie lo ha hecho ni ela

porque todo el mundo sabe que es falso este debate que estamos teniendo aquí por eso nosotros no hemos hecho una enmienda es evidente que estamos a favor

pero es que este no es el debate esto no es lo que ustedes nos han traído aquí la representante de bildu

yo he apuntado textualmente algunas de sus frases claro dice usted

y entonces para ustedes literalmente nos dice lo más preocupante para bildu es que confebask niegue el documento

o que no exista qué es más preocupante para bildu qué es más preocupante que no existe el documento

porque lo que querrían es que existiera el documento claro y luego nos dicen no es suficiente

además de decir que no es suyo para que a usted le suponga algo y no estemos hoy aquí hablando no sé exactamente de qué yo no sé de qué estamos hablando

qué es más preocupante a lo mejor bildu lo que quería es que existiera ese documento

o el tema que se está proponiendo aquí los adalides de la libertad sindical es que a lo mejor lo que hay que hacer es ilegar a confebask no sé

está claro que no es el documento porque les da igual que exista o que no exista porque más preocupante que que exista es que no exista y mientras tanto pues bueno

o lleven muchos años ausentes de los órganos y consejos de participación institucional es que por un lado han entrado en la dinámica de boicotear con éxito

y por otro dedican buena parte de sus esfuerzos a cuestiones ajenas a los fines que les son propios como todo lo referido al tren de alta velocidad o que solo muy colateralmente tienen que ver con la acción sindical iniciativas legislativas sobre cláusulas sociales o en materia fiscal gero esaten du por supuesto dichas organizaciones pueden libremente dedicarse

deberían embestidas de lo que realmente

nada en absoluto lo que resulta un poco irritante

para provocar un ruido y una humareda que no se corresponde con la esencia verá esto pasa porque aquí

de qué estamos hablando lo que diga confebask en un sentido o en otro lo digo con franqueza a mí me importa un comino los derechos y las libertades públicas

en leyes que son lo que dan garantía y seguridad jurídica en una sociedad plural compleja y diversa

tiene que haber de todo mejores peores buenos malos y medio pensionistas

son las leyes leyes que aquí no han sido cuestionadas en ningún momento leyes que recogen todos estos grandes conceptos de derechos y de libertades y por lo tanto

por eso hacía hincapié en el carácter un tanto infantil de este asunto

el niño que va señorita que es que este ha dicho no que yo no he dicho y vienen aquí no hombre no es que esto es un poco un poco

yo le felicito a ela por sus resultados y por

digamos frutos de la estrategia que sigue no puedo felicitar a los cientos de miles de trabajadores vascos que con esa mayor representatividad no tienen cobertura de convenios colectivos

es decir yo reconozco la legitimidad de los sindicatos representativos

con lab conforman una gran mayoría que pueden hacerla valer pero no pueden pretender que el mundo se pare porque ellos quieren bajarse

lo irritante es tratar de perturbar porque si hablamos de libertad sindical hablamos de libertad sindical pero es que este asunto no cuestiona para nada confebask se puede poner

son las leyes las que tienen que garantizar los derechos y como digo hasta el momento la ley que regula todo esto no ha sido cuestionada

y todo lo demás se lo digo sin acritud pero son pájaros y flores eskerrik asko itxaso jauna

nos dice usted que le creemos más a confebask que a ela

sobre los documentos de confebask habrá que creerle más confebask sobre los de ela a ela

dice que no es suyo y usted le dice que no le basta

es un debate de sordos nadie puede probar lo que no existe

voy a repetir lo mismo que le dije al representante de ela en la comisión esto es un debate falso y ficticio

que el documento es real vamos a suponer que el documento

vamos a suponer que esas eran las alegaciones y están en el decreto del gobierno se han asumido las puede asumir puede un decreto modificar una ley orgánica

es imposible aunque si fuera verdad es imposible

en los últimos dos años en este parlamento en el que se habla de un decreto del gobierno del pp y no se pone a parir el decreto del gobierno del pp sino las alegaciones que ha hecho una de las partes

debo felicitar al gobierno del pp por primera vez porque hay unanimidad en que lo ha hecho fantástico al no recoger las alegaciones que no existían en un documento que no existía

pero por lo menos no nos hemos equivocado ni siquiera en eso

y como le dije también al representante de ela si es que el representante de ela tenía interés en oír de la propia confebask que se lo digan a el personalmente a la cara que se documento no existía pues podía haber ido a la mesa sectorial y preguntárselo lo que es donde está es absurdo

cuando ya lo ha dicho hace dos meses donde correspondería

a nuestro entender ustedes pueden pensar evidentemente lo contrario pero yo le voy a recordar

de esa ley de libertad sindical solo una cosa es decir

sindicatos sin autorización previa y es una ley orgánica es que ningún decreto

va a ocurrir por lo tanto podemos seguir aquí hablando de la nada o de la no nada como me dice usted así empiezan las leyes mordaza las leyes mordaza empiezan

con una dotación presupuestaria inicial de dos coma cinco millónes de euros y que permitían hacer obras de rehabilitación por valor máximo

los datos en relación a la gestión llevada a cabo por el actual departamento de vivienda

a dar al acceso a la vivienda en alquiler y al objetivo fundamental de disminuir el número de viviendas deshabitadas

lo cierto es que en los dos últimos años los programas de captación de vivienda vacía existentes en la comunidad autónoma no están dando los resultados previstos en dicho plan

solo no alcanza los objetivos establecidos en el plan director de la vivienda sino que cuenta con menos viviendas que en diciembre de dos mil doce

que puso en marcha el gobierno anterior poco antes

y que tiene como objetivo principal facilitar que las viviendas vacías de titularidad privada se incorporen al mercado del arrendamiento a un precio asequible para las personas arrendatarias esto no acaba de arrancar y tampoco se han venido cumpliendo los objetivos establecidos por el mismo para el plan director de vivienda mientras tanto en el actual coyuntura económica el número de demandantes de vivienda en alquiler supera en mucho al número de demandantes de vivienda en compra

por ello y teniendo en cuenta que si bien es cierto que en el plan director de vivienda dos mil trece dos mil dieciséis se hace hincapié en la búsqueda de fórmulas que faciliten el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a la necesidad de reducir el parque de viviendas vacías existentes en la comunidad autónoma y al fomento de acciones de rehabilitación sobre el parque existente

también lo es que desde el departamento de empleo y políticas sociales no se ha hecho referencia alguna a tener intención de implementar ningún programa concreto en este sentido para nosotros la puesta en marcha de un programa de estas características puede ayudar a cumplir varios objetivos movilización de vivienda vacía hacía el alquiler social que contribuiría a impulsar el acceso a la vivienda de las personas que más lo necesitan

generación de empleo tanto directo como indirecto en una actividad económica la rehabilitación que frente a la puesta exclusiva por los nuevos desarrollos residenciales supone un menor consumo de recursos económicos y naturales

gracias presidenta y que conste que lo hago por todos ellos existen estudios que dicen que por cada euro

económica adicional sino que por cada puesto de trabajo directo se generan uno coma siete nuevos empleos además la inversión para crear un nuevo empleo en rehabilitación

es inferior a la requerida en el resto de actividades constructivas o industriales y la de la rehabilitación es uno de los sectores con mayor participación local en los beneficios que genera

por estas razones presentábamos nuestra iniciativa que ha desembocado en una enmienda de transacción con el partido nacionalista vasco a quien yo agradezco su disposición al acuerdo puesto que partíamos conpresupuestos análogos por lo tanto

celebrar el acuerdo y la transacción y esperar que el resto de los grupos

nuestro grupo ha presentado una enmienda que coincidía como bien dice el señor itxaso

y coincide también con lo que el gobierno está estudiando es una experiencia piloto para movilizar la vivienda vacía y lograr que se incorpore al parque de viviendas de alquiler se trata de que los propietarios de pisos cerrados los cedan gratis a la administración durante un periodo de tiempo a cambio de que el gobierno haga las obras

cuestiones de accesibilidad una especie señorías de rehabilitación por renta algo que

ahora se trataría de incorporar esta forma de actuar hacia la administración pública competente en materia de vivienda

es que esta forma de actuación no haya podido debatirse en el seno de la ponencia encargada del estudio de la proposición de ley de vivienda y no precisamente por falta de interés de nuestro grupo

euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza sí pues con su permiso también desde el escaño señora presidenta porque si
el proponente ha sido tan breve y el enmendante pues también no se trata de que nos extendamos los demás la verdad es que

le iba a votar que sí a su iniciativa voy a votar también a la enmienda porque no tenía ni un pero

consideramos desde el grupo popular que es una muy buena iniciativa porque cumple todos los objetivos que usted ha dicho poner la vivienda vacía en el mercado

el instrumento jurídico más demandado en este momento por los vascos para acceder a la vivienda y supone que el parque de viviendas tan antiguo que tiene

rehabilitado y todo ello como siempre hemos insistido desde el grupo popular mediante el fomento y no mediante la penalización de la misma forma que íbamos a votar a la iniciativa original afirmativamente también lo vamos a hacer a la enmienda y solo esperar que esto no se quede aquí
y que este mandato parlamentario sí se cumpla y sí se ponga en marcha nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

efectivamente bajo y hablaré más despacio para consumir el tiempo porque no puedo responder

volumen de objeciones si usted hubiera presentado una enmienda aunque sea con el comodín de viva el alquiler

hablar de esto amplia y sobradamente para haber depurado las diferencias de criterio porque efectivamente nosotros también somos partidarios de la ley una vez más

la que incorpore efectivamente todas las políticas en las que venimos estando de acuerdo no solo ustedes y nosotros sino buena parte también del resto del arco parlamentario

lo cierto es que al contrario de lo que plantea el señor aldaiturriaga si este tema y otros muchos los hubiéramos llevado a la ponencia

en fin podría ser la historia interminable por lo tanto en el ejercicio en el ejercicio habitual de un grupo de oposición que es estar digamos

que justo coincide con el trámite de la ley y que tiene por objeto efectivamente también dinamizar y acelerar su finalización yo espero que todas esas objeciones las podamos depurar

en fin serenamente y por lo demás agradecer también a la señora

de la iniciativa pero debo decir que no es mía sino es del grupo por eso es una buena idea nada más y muchas gracias beste norbaitek

un día para reclamar a la sociedad ya que si bien es cierto que hemos logrado dar pasos todavía es muy largo el camino para la consecución de una igualdad efectiva entre mujeres y hombres

para ello vemos necesario urgente un cambio de valores que propicie esa transformación social que acabe para siempre con la discriminación laboral de las mujeres

con el desigual reparto de trabajo productivo y reproductivo y con la violencia machista hacia las mujeres la consecuencia más dura y cruel

precisamente por la dificultad de este cometido invocamos a todos y a cada una de las personas que formamos parte de esta sociedad para que en nuestra vida diaria seamos capaces de construir con nuestras decisiones y comportamientos esa igualdad tan

pero más allá de esto es un día para comprometernos por eso queremos corroborar nuestra postura tenemos que continuar de manera firme impulsando acciones todas las acciones necesarias para lograr la equidad entre mujeres y hombres

que ponga la vida en el centro de la economía y al revés guztiontzat eskubide berberak lortzeko bidean aurrera egiteko beharrezkoa da elkarlana